señor lehendakari sabemos lo que propone eh bildu y no nos extraña propone derogar la ley

euskadiko eguna parece coherente con su postura no cree ni en este ni en otro estatuto quiere la independencia de euskadi quiere la conformación de la gran euskal herria y quiere romper nuestros vínculos políticos con el resto de españa eh bildu desprecia nuestro marco de convivencia desprecia aquello que nos une

a la sociedad vasca este es su proyecto político a partir de ahí parece coherente que pretenda que el día veinticinco de octubre deje de ser el día de euskadi porque fue ese día cuando se aprobó el estatuto de gernika aquello que

garantiza nuestra convivencia y nos une al resto de españa propone además declarar festivo el día internacional del euskera aunque es un idioma que no lo conoce ni lo habla la mitad de los ciudadanos vascos nos preocupa más la posición política del partido nacionalista vasco aunque tampoco nos sorprende

disgregadores de eh bildu podemos recordar las palabras del gobierno vasco en boca del consejero de empleo y asuntos sociales no hace ni quince días

el consejero añadió que se produciría división también en el caso de promover su derogación hoy el partido nacionalista vasco propone su derogación el consejero dijo que se produciría división también en el caso de promover su derogación dirigiéndose al señor urizar el consejero le preguntó

tienen poco que ver con las preocupaciones de la ciudadanía añadió este debate genera nuevamente división traslada a la sociedad un mensaje de conflicto

sino que se los creamos hoy el partido nacionalista vasco el grupo nacionalistas vascos decide crear problemas a la sociedad vasca en palabras del propio

el consejero mostró reiteradamente su desacuerdo con la ley es cierto pero insistió en que no creemos que sea el momento de reabrir de cara al año dos mil catorce un nuevo debate que creemos que no conecta en estos momentos directamente con las necesidades que tiene la sociedad esto dijo el consejero porque hacer un debate público para derogar esa ley llevaría solamente a evidenciar solamente la diferencia y el desacuerdo bien

apoya la diferencia y el desacuerdo el consejero hizo referencia al programa legislativo del actual gobierno y afirmó que en ese programa legislativo este gobierno no tiene marcadas entre sus prioridades un proyecto de ley que modifique la ley y anunció que el próximo día veinticinco de octubre de dos mil catorce será fiesta nuevamente en el país vasco por tanto en nuestra opinión es obvio que el partido nacionalista vasco se ha dejado arrastrar nuevamente por eh bildu mostrando de ese modo

ahí está su enmienda ahí está su proposición de ley mañana realizaremos una pregunta al lehendakari sobre la materia para ver exactamente qué es lo que opina el gobierno en este asunto y si ha cambiado de opinión o no

repetimos los mismos argumentos ya expuestos el día cuatro de diciembre del año dos mil nueve y posteriormente también cuando se debatió y se aprobó esta ley aunque upyd es crítico con muchos del actual estatuto de gernika

como proponemos reformar sin ir más lejos la constitución española una cosa no quita a la otra porque este partido es profundamente respetuoso

democráticamente con las normas básicas que garantizan nuestra convivencia aunque pretendamos modificarlas y hacerlo por supuesto a través de los mecanismos legales

básica que en su momento ratificó la mayoría de los vascos y que nos permite convivir juntos y unidos al resto de españa por ello upyd apoyó la iniciativa parlamentaria que decidió que el veinticinco de octubre fuera día festivo en el país vasco no fue

una imposición fue una ley aprobada en este parlamento eso no es en absoluto una imposición y por ello upyd defiende que el día veinticinco de octubre siga siendo festivo en el país vasco insisto

en nuestro caso propongamos y es cierto y defendamos es cierto su reforma no para alcanzar nuevas competencias sino incluso para devolver algunas esto carece de importancia esto no es tan importante en el debate de hoy lo importante es que reconocemos

por lo que representa a día de hoy aquello que nos permite convivir juntos y unidos al resto de los ciudadanos españoles esto es para nosotros lo más importante y por eso hay que prestigiar el estatuto

cambios y reformas para actualizarlo por ello apoyamos la iniciativa parlamentaria del año dos mil nueve y rechazamos

emanado de la constitución española es nuestro marco jurídica actualmente vigente y nuestro marco de convivencia es decir de que podamos convivir juntos vascos con ideas distintas y de que podamos disfrutar de los derechos de los que disfrutamos porque entendemos el valor del estatuto independientemente insisto de que haya quien pretenda modificarlo nosotros mismos proponemos modificarlo pero entendemos perfectamente el valor

del asunto por ello upyd apoyó aquella iniciativa parlamentaria que debatimos el día cuatro de diciembre del año dos mil nueve por eso aprobamos la ley y como forma también de prestigiar nuestro marco jurídico constitución española y estatuto de gernika y las instituciones emanadas también este parlamento es ciertamente llamativo que tuviera que ser una mayoría política distinta a la representada por el nacionalismo vasco la que aprobará iniciativa es ciertamente llamativo que el nacionalismo haya preferido siempre festejar sus fiestas particulares y que sin embargo nunca propusiera la celebración de un día que objetivamente representará a todos los ciudadanos de euskadi

euskadi gracias precisamente a la constitución española y el estatuto de gernika fueran los que se opusieran en su momento a esta iniciativa

arrastrados por eh bildu pretendan derogar esta ley pero la explicación en fin puede ser sencilla el nacionalismo vasco ha considerado siempre que el marco jurídico que nos habilita como sujeto político

no es más que un paso previo y un instrumento hacia

en fin por estas razones nosotros obviamente votaremos en contra de la moción planteada por eh bildu y en contra también de la enmienda planteada por el grupo nacionalistas vascos

instalada la política vasca en la que vivimos lamentablemente instalados está llena de demasiadas contradicciones y paradojas porque

una fiesta no debatimos solo eso y

de los que lo hablan y de los que no sean el cincuenta y uno por ciento el cincuenta más uno el euskera es patrimonio cultural de esta tierra y de todos los vascos de los que lo hablan y de los que no

como la planteada hoy por eh bildu y secundada obedientemente por el partido nacionalista vasco estaría bien que quienes hoy aquí representamos hoy a la ciudadanía vasca reconociéramos empezáramos reconociendo también lo obvio empezar reconociendo que la creación de este parlamento nace tras la aprobación del estatuto de gernika

no es opinable es una verdad jurídica y es una verdad aplastante pero vista nuestra reciente historia y comportamientos también del presente

que no alcanzo a comprender que no alcanzamos a comprender por mucho

se repita aquella fecha del veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y nueve es la que otorga como digo legitimidad a este parlamento es la legitimidad de quienes hoy lo representamos

es la legitimidad que otorga el estatuto de autonomía que crea y otorga también legitimidad a nuestras instituciones y que configura una euskadi moderna basada y sustentada en valores cívicos y democráticos

contribuir a llamar a las cosas por su nombre a reconocer qué y por qué estamos hoy aquí o lo que es lo mismo

sin cambiar la historia contándolo tal y como fue que si hay algo que une a los vascos aquí representados que si hoy podemos hablar de autogobierno

este entramado institucional que da sentido a euskadi es gracias al consenso entre diferentes es gracias al pacto es gracias

no siempre mantenida es cierto pero es gracias al estatuto eso es lo que celebramos el veinticinco de octubre

es la euskadi del estatuto de autonomía la euskadi a partir de mil novecientos setenta y nueve la de los ciudadanos la euskadi que da amparo y acepta nuestra pluralidad y no es la euskadi de los mitos ni de la prehistoria ni de sabino arana ni de ninguna otra cosa

existen variadas confusas antagónicas

que existen distintos sentimientos sobre euskadi sobre lo que somos

pero solo hay algo que nos une a todos y ese algo es el pacto es la aceptación de renuncias

es la aceptación del imperio de ley por encima del imperio de las opiniones

es todo lo que refleja este parlamento y eso es lo que celebramos el veinticinco de octubre

la pregunta que cabe hacerse es qué importa que aquella votación del veintidós de abril del dos mil diez unos partidos votaron a favor la mayoría entonces y otros en contra de crear la festividad de euskadi el veinticinco de octubre no es esa la cuestión

poner en valor aunque sea demasiado obvio que el punto de encuentro de los vascos es el estatuto de autonomía que el único punto de encuentro hasta la fecha es un estatuto de autonomía el estatuto de gernika en una sociedad

en una sociedad demasiado separada por los sentimientos en una sociedad demasiado saturada de rupturas

de enfrentamientos una sociedad agotada de enfrentamientos

se fundamentan en lugares de encuentro a los que le otorgan valor jurídico en pactos políticos que refrendan sus parlamentos la nuestra

emprender un camino de pacto ciudadano que a algunos les gusta más y a otros les gusta menos

y por tanto merezca reflejarse por eso celebramos el veinticinco de octubre

nos merecemos poner en valor y celebrar el encuentro

poner en valor y celebrar el encuentro también como forma de rechazar el enfrentamiento ese enfrentamiento que ha agotado a esta sociedad que ha agotado a este país algunos

y lo hacen además también divididos entre distintas familias que dan cuerpo al nacionalismo vasco y esa es una celebración legítima

pero las comunidades modernas no celebran sentimientos los sentimientos que son siempre de parte que no unen

las comunidades modernas celebran su madurez ciudadana y los acuerdos de convivencia que certifican a través del pacto por encima de sentimientos las comunidades modernas celebran la razón y por qué se buscan problemas añadidos para celebrar algo tan obvio como es el día oficial de la comunidad autónoma vasca

qué otro día podría simbolizar mejor el único y más próspero punto de encuentro entre el pluralismo y la complejidad de lo vasco por qué extraña e incomprensible razón qué especie

para que euskadi no pueda ser una tierra en la que sus representantes políticos

qué hemos hecho para merecer esto que eh bildu que representa una ideología revolucionaria que no cree en el estado de derecho ni en sustituciones que quienes no creen ni en el pacto ni en la pluralidad de la sociedad si no es desde la imposición de su particular visión excluyente de lo vasco no entienda esto es lógico es esperable

lo que de verdad llama la atención señor lehendakari es que de verdad el partido nacionalista vasco va a volver a jugar desde las instituciones

a la división de nuestra sociedad de verdad que vamos a eso una vez más de verdad que el partido nacionalista vasco

por eh bildu de verdad una vez más de verdad que en estos ya largos meses de gobierno se estrenan ustedes con un no

ustedes con un no a la celebración del pacto del encuentro entre vascos

el no con la difícil y compleja situación por la que atravesamos por la que atraviesa euskadi con un paro preocupante con una situación económica crítica

con un descrédito creciente de los políticos y con una ciudadanía que cada vez confía menos en nosotros ustedes de verdad

al encuentro con un no a la celebración del entendimiento se estrenan de verdad rompiendo y abundando en lo que nos separa es un poco de locos reconozcámoslo que en pleno siglo veintiuno estén ustedes ciertamente desdibujados

lo que realmente somos no les veíamos nosotros en esa vuelta al pasado señor lehendakari se estrena usted

la gestión para presentarnos como primera medida

la eliminación de algo tan asumido por la sociedad como normal como es la celebración del veinticinco

de festividad en euskadi es como si les hiciera daño que la izquierda

símbolos mitos siempre los suyos pero no buscando los de todos no aceptando los de todos

con ese misticismo nostálgico y plagado de falsificaciones de ensoñaciones de redentores

lo que hacen es alejarse y alejarse cada vez más de euskadi se alejan cada vez más de la euskadi global se alejan cada vez más de la euskadi del siglo veintiuno la que avanza a pesar de ensoñaciones la que busca un futuro abierto no endogámico

en viejos enfrentamientos y se alejan de una euskadi que quiere homologarse que tenemos derecho a las sociedades modernas

de la euskadi no amarrada a los debates patrioteros de la euskadi que se distancia

los nuevos tiempos tiempos desde luego más cercanos a la euskadi del estatuto

que a la euskadi de akelarres y de ensoñaciones místicas a la euskadi

que recuerda a lo que recuerda a patrioterismos caducos en la aldea global no es nuevo

no es nuevo es cierto pero le reconozco que no dejamos de sorprendernos señor lehendakari

que le permite gobernar que le ha permitido gobernar a su partido también durante casi treinta años en euskadi se mueven ustedes en una ambigüedad

que cada vez funciona menos porque al mismo tiempo que gozan y gobiernan este entramado institucional al mismo tiempo que hacen eso recelan de su legitimidad no festejan su legitimidad

esa ambigüedad también a ustedes se les agota por eso

celebramos el nacimiento de algo nuevo algo nuevo que supuso un antes y un después para euskadi amaitzen joan mesedez celebramos que decidimos poner

la modernidad el punto de encuentro entre vascos y celebramos que intentamos rechazar el enfrentamiento celebramos las renuncias parciales por la convivencia de todos y es una pena que ustedes estén

ha basado su intervención en una especie de magnífico alegato a favor del euskera de su tradición milenaria de lo que supone para el patrimonio histórico y cultural del país

lo que ocurre es que usted con eso lo que ha hecho es un magnífico ejercicio de disimulo para no entrar

que se ponga o no se ponga el día internacional del euskera como día de la festividad

como día de euskadi y por lo tanto aquí se disimula se adorna con palabras amables y no se entra en el fondo de la cuestión que es que lo que ustedes piden es que

un día que significa el mayor punto de encuentro político que se ha alcanzado en euskadi hasta la fecha y con su iniciativa los representantes políticos de eso que se ha venido en llamar el parlamento de la calle

que parece ilustrar cuáles son sus verdaderas prioridades sociales un debate con el que tal vez pretende hacer buena su idea de que este es un parlamento inútil que no tiene nada que decir a la gente y menos aún a quienes peor lo están pasando en este país

para dar respuesta a los problemas de quienes más sufren la crisis de este país

que consagra el veinticinco de octubre como día de euskadi algo que no me cabe duda que los cientos de miles de trabajadores que están inquietos por la renovación de sus convenios

pero se ve que la preocupación social de quienes dicen representar a la calle

a una tentativa de huelga política como la que secundó de manera entusiasta hace una semana según sus patrocinadores para defender los intereses de los trabajadores vascos de acuerdo con la realidad para defender con lenguaje sindical un proyecto soberanista que tiene muy poco que ver

puro y duro es por lo que eh bildu nos presenta ahora esta moción que ha tenido el efecto perverso de arrastrar al partido nacionalista vasco

que también hemos conocido para nuestra desgracia en este país en tiempos pasados

quienes supuestamente representan la voz de la calle despide esa especie de aroma rancio de lo que es anacrónico y debiera estar en el baúl de los malos recuerdos nos han traído aquí una especie de cadáver maloliente del pacto de lizarra pero ya no en clave de tragedia

aunque esto no deja de tener su cierto patetismo teniendo en cuenta lo que con este debate por desgracia vamos a reproducir cuando parece más necesaria que nunca la unidad de partidos e instituciones

absoluta en este momento nos encontramos con un debate artificial en el que el partido del gobierno

populares de euskadi se ponen de acuerdo pese a sus diferencias en dividir otra vez a la sociedad vasca por motivos simbólicos e identitarios no tiene esto nada que ver con un verdadero diálogo de país como el que los socialistas vascos estamos impulsando para llegar a acuerdos de calado

sobre los servicios públicos sobre la reforma de las administraciones públicas y una fiscalidad que permita mantener el impulso a la actividad económica

son las claves de nuestro futuro como país lo demás lo que hoy estamos por desgracia debatiendo otra vez aquí no pasa de ser una anécdota que esperemos no tenga mayor recorrido

que no podemos ni queremos pasar por alto porque esta esta es una de esas propuestas que se plantean cuando hay un gobierno débil un gobierno más pendiente de quienes le disputan la hegemonía del campo nacionalista

no ha sido solo incapaz de tomar decisiones y suscitar consensos sino que además parece ser que tiene dificultades incluso para llegar a acuerdos con su propio partido

en el parlamento que no está entre sus prioridades derogar la ley sobre el día de euskadi y pocos días después tiene que desdecirse cuando su propio grupo político

anuncia una proposición de ley precisamente para eso para derogar la ley actual un anuncio que por utilizar una expresión usada por el actual lehendakari viene a ser un auténtico golpe de mano del grupo nacionalista contra su propio gobierno porque esto es de verdad una desautorización en toda regla señor egibar de su partido

y dicho sea de paso también un golpe a la credibilidad del código ético que el propio gobierno vasco se ha dado hace muy pocos días porque quiero recordar que en uno de sus puntos

que la honestidad en el ejercicio del cargo público implica ser capaz de transmitir veracidad credibilidad y de no recurrir al engaño o a la distracción

para decir lo contrario días después como hizo el consejero de empleo

veracidad y credibilidad o todo lo contrario de verdad creen que alimentando este debate

a la distracción o al encubrimiento de los verdaderos problemas que tiene este país que no son estos desde luego dicho esto

que nuestro grupo evidentemente va a votar en contra de esta iniciativa porque la verdad no acabamos de entender cuál es la razón por la que el partido nacionalista vasco va a apoyar

y que tiene su base precisamente en este estatuto que celebra el día veinticinco se oponga a celebrar por ley el día del estatuto como fiesta

y un gobierno estatutario puedan oponerse a celebrar el día en que este país recuperó su autogobierno y nada menos después de cuarenta años de dictadura y ustedes fueron parte fundamental de aquel acuerdo estatutario y con el autogobierno sus instituciones sus competencias el concierto económico ese que nos empeñamos en tener que defender cada poco tiempo

que nos permiten construir política económica y socialmente el país y no entendemos que desde las instituciones vascas tengamos que ocultarnos a nosotros mismos

con el estatuto en la mano independientemente de la valoración que a ustedes les merezca

o parcialmente el caso es que hasta aquí hemos llegado y tenemos lo que tenemos no gracias a otra cosa

esa que todos nos empeñamos en decir que tenemos que defender a capa y espada en momentos de crisis

y nos sentimos legítimamente orgullosos de ellas unas políticas de protección social que son referentes para toda españa

gracias al estatuto unas políticas de innovación y de apoyo al tejido productivo

de la sanidad de la educación del empleo de la innovación y todo eso

de eso que ustedes no entiendo por qué se niegan a querer celebrar

y tenemos una policía propia que es posible gracias al estatuto y una televisión pública vasca que es posible gracias al estatuto y un gobierno vasco y un lehendakari que lo son

y un euskera vivo cada vez más vivo señor urizar gracias también

no lo entendemos y no podemos aún entender que el grupo nacionalista venga aquí a hacerles la ola a quienes durante tantos años tuvieron como único objetivo cargarse el estatuto

y en el momento además en que ese objetivo político de la izquierda abertzale resulta que ha fracasado

el autogobierno las instituciones de euskadi ustedes se alían con ellos para quitar de en medio una fiesta que parece molestarles no sé por qué y lo que nos parece una broma

nos den como razón fundamental que el día de euskadi parece ser que es una fiesta que divide a los vascos

quien divide este país pues puede ser como decía el señor semper la celebración del aberri eguna

cada uno por su lado y con elementos y discursos radicalmente distintos y nosotros seguimos pensando que el día del estatuto es un día de celebración por lo que representa para este país y luego piensen ustedes que les falta un poco que hay que desarrollarlo más que tenemos que reformarlo pues muy bien pues de acuerdo pero hasta tanto se produzca

el más importante que hemos tenido jamás los vascos es este y por eso no entendemos esa deriva o ese síntoma o ese aroma de que algo puede empezar a cambiar en la estrategia política del partido nacionalista vasco nosotros vamos a seguir defendiendo el amplio consenso político y social que el estatuto ha ido haciendo

a pesar de los desencuentros y seguiremos comprometidos con la defensa

como lo ha hecho en el pasado todo eso el pacto el acuerdo los avances sociales y políticos de este país es lo que encarna para los socialistas vascos

la celebración del veinticinco de octubre y por eso queremos que siga siendo una referencia para el conjunto de la población vasca eskerrik asko pastor jauna erantzunen txandan

les decíamos ustedes están aprovechando de una situación de una mayoría porque ahora sí que hemos descubierto señor pastor que el año dos mil diez no había crisis

estaba entre las primeras preocupaciones modificar el calendario electoral o

no dividía a la cámara y ustedes eran conscientes de que había parte de la sociedad no estaba representada en esta cámara

y había otras formaciones políticas estaba aralar

pero ustedes se empeñaron en imponer aquella fecha

de imposición lo hacemos además desde la perspectiva del partido popular que bueno el señor semper ha hecho un alegato de lo que significa el estatuto

lecciones de manual del buen orador pero buscando esos espacios comunes que no dicen nada y usted tiene que abordar la cuestión de fondo

ustedes proponen la celebración del día del estatuto cuando la sigla matriz de ustedes alianza popular la de sus mayores que algunos todavía siguen en el partido popular en el referendum del estatuto de autonomía pidieron no

a aquel estatuto pidieron votar no a la sociedad y la evolución efectivamente

está basada en el incumplimiento sistemático de ese estatuto

en un estatuto incompleto incumplido y el señor gorka maneiro que dice que él con las diferencias que tenga no si usted está pidiendo la derogación del concierto económico y está pidiendo no se qué

propone como día de celebración y el partido socialista

después del fallido golpe de estado que en palabras de dirigentes del partidos socialista de aquí de allá dice que el estatuto fue una concesión política por bien de paz

el diccionario tiene nombre propio y es sarcasmo eso es pretender

y dijimos no a la proposición de ley y en este momento diremos sí a nuestra proposición de ley

derogar una imposición y por nosotros ese debate va a durar un minuto derogar una imposición eskerrik asko

gracias presidenta no sé si mañana

a mi pregunta sobre la derogación de este día festivo o si será el señor consejero cualquiera de los dos va a tener ciertamente problemas para explicar el cambio de postura desde luego si lo hace el señor consejero doblemente

hace apenas quince días no sé si va a ser de nuevo el consejero quien mañana responda

o para tratar de disimular o si en este caso será el lehendakari quien escuchado

lo que tenga que plantear en relación a la postura de este gobierno en relación a la proposición de ley que plantea ahora el partido nacionalista vasco lo cierto señor lehendakari es que hoy el partido nacionalista vasco otra vez decide denigrar el estatuto

qué tiene usted que decir ante esto señor lehendakari hoy en partido nacionalista vasco decide otra vez despreciar el estatuto

que nos une a los vascos y aquello que nos une también junto con la constitución española al resto de los ciudadanos españoles porque esto también

y es la constitución española aquello que permite que tengamos este parlamento que tengamos este gobierno y que usted señor lehendakari sea lehendakari efectivamente aunque propongamos su reforma es el actual

es el actual marco de convivencia y nosotros lo respetamos también queremos

pero eso no impide que incluso nos autodenominemos constitucionalistas porque creemos en la constitución española y creemos también en el estatuto de gernika con todas las modificaciones que sean necesarias pero creemos porque son los actuales marcos jurídicos que hacen que

podamos convivir unidos y podamos convivir también unidos al resto de los ciudadanos españoles aunque planteemos reformas y en algún caso reformas profundas hoy señor lehendakari

arrastrado sin duda por eh bildu denigra y desprecia nuestro marco de convivencia aquello que conforma nuestro marco de convivencia junto

española aquello que permite que tengamos este parlamento aquello que permite que usted sea lehendakari aquello que permite que tengamos un gobierno vasco usted ustedes lo denigran esto es ciertamente triste

de una vez en lo importante que impulse medidas para salir de la crisis

las reformas que euskadi necesita para modernizarse y para defender los intereses de los ciudadanos y para resolver sus problemas en lugar de crearlos porque ya son seis meses

ustedes parados sin impulsar ni una sola reforma de calado ni una de esas reformas que euskadi necesita para salir de la crisis y modernizarse en fin

lo dijo el gobierno se produciría división en el caso de promover su derogación el partido nacionalista vasco promueve hoy su derogación el gobierno dijo hace quince días que se produciría división

traslada a la sociedad un mensaje de conflicto da la impresión de que no le resolvemos los problemas sino que se los creamos el partido nacionalista vasco decide crear nuevos problemas en lugar de resolverlos esto fue lo que dijo el gobierno hace menos de quince días el consejero

dijo que hacer un debate público para derogar esa ley llevaría solamente a evidenciar nuevamente la diferencia y el desacuerdo bien el partido nacionalista vasco comandado por el señor egibar arrastrados por eh bildu impulsar el debate público para derogar esa ley y obviamente esto únicamente puede traer la diferencia y el desacuerdo tal como dijo el propio gobierno

ya digo ustedes vuelven a denigrar aquello que nos une aquello que hace que podamos tener este parlamento aquello que hace que podamos tener este gobierno nuestro marco de convivencia aquello que nos une a los ciudadanos vascos y que junto con la constitución española nos une también al resto de los ciudadanos españoles

un grave error un nuevo error en la ya larga lista de errores del partido nacionalista vasco gracias eskerrik asko maneiro jauna

su dilatada trayectoria parlamentaria me califique o califique mi intervención como de buena oratoria es para mi un verdadero

de buen orador debería existir un manual también de buen político o buen parlamentario

a mi juicio y seguro que en esto también discrepamos que busca el encuentro

que busca permanentemente esas cosas que mejoran la sociedad que no son la ruptura señor egibar que no son el distanciamiento entre unos vascos y otros

porque usted lo sabe bien incluso en su mismo grupo parlamentario entre usted y por ejemplo el lehendakari hay diferentes sentimientos y lo que hacemos los políticos es trascender

para buscar a través de la razón esos espacios de convivencia que en este caso concreto nos dan las normas

y lo que le he intentado explicar antes es que independientemente de cuestiones menores o mayores

el estatuto de autonomía lo que significó para una sociedad como la nuestra tan

tan agotada de distanciamientos tan aburrida

fue poner la razón por encima de esas cuestiones el acuerdo el entendimiento esas cuestiones que pone o que debería de poner el manual de buen político de buen estadista o de buen parlamentario que le recomiendo que lo lea

porque aquí hay muchas formas de afrontar la política en la vida hay muchas formas de afrontar la política en euskadi

que es igual que bildu igual que el señor urizar pretender amarrarnos en el pasado

que si el franquismo que si los cuarenta años que si ap

trasciendan de los manidos debates y permítanos a los vascos afrontar un futuro mejor de lo que ha sido el pasado

y lo que ponemos en valor el veinticinco de octubre es precisamente eso es poner en valor el futuro algo que fuimos capaces de una manera inédita de acordar los vascos

cuántos acuerdos hemos sido capaces de llegar en este país en estos treinta y tantos años a cuántos digo de calado de trascendencia de aquellos que marcaron un antes y un después al menos acuerdos

para uno que existe como punto de encuentro como unión

de nosotros tenemos pero como punto de encuentro a través de la renuncia también

y los setenta y cinco parlamentarios que nos sentamos aquí estamos sentados gracias al estatuto de autonomía y los vascos tienen un marco de referencia legal que nos permite afrontar

gracias a normas a leyes que configuran nuestra comunidad autónoma que le dan legitimidad política y que proyectan a los vascos hacia un futuro mejor

ha sido ese pasado que ustedes tanto recuerdan y tanto añoran nosotros no añoramos el pasado añoramos y buscamos un futuro mejor

en impedir que consigamos y ya está bien de que las ensoñaciones nacionalistas

ya está bien de que las ensoñaciones del partido nacionalista vasco en este caso empujado por bildu

a confrontar ideológicamente con ustedes dos modelos de país el suyo el de el partido nacionalista vasco que mira permanentemente al pasado y que nos quiere amarrar a un pasado de ensoñaciones y un proyecto que es el que representa el partido popular que quiere construir un futuro para euskadi de todos poniendo en valor lo que nos une

buscando lo que nos une que es mucho quizás no a ustedes y a nosotros pero sí a los vascos

cuando ustedes se suban al monte con estos señores no le quepa ninguna duda que estaremos nosotros para ser una referencia para euskadi y para los vascos muchas gracias eskerrik asko

fueron ustedes los que hace pocos días dijeron

acompañaban a los trabajadores de ela y lab por las calles de euskadi

cosas tontas de radares y de cosas que no le importan a la gente y a usted le parece de verdad que esto es algo que estaba en la cabeza de aquellos miles de personas que se manifestaron por las calles de euskadi aquel día a usted le parece que eso responde

esto que ustedes nos ha traído hoy aquí me parece sinceramente que no y le voy a decir una cosa con mucha tranquilidad pero con mucha firmeza no le voy a admitir a usted ni le voy a permitir que dude

sí sí sí usted ha dudado de que nosotros estuviéramos apoyando realmente como décimos

pero le diré fueron dos consejeros socialistas josé ramón recalde y fernando buesa los que más hicieron por desarrollar el euskera en la educación

y el otro casi por lo tanto no vamos a consentir que nadie dude sobre nuestra voluntad nuestro empeño y nuestra defensa

de festividades yo entiendo perfectamente que ustedes no se sientan representados por el estatuto ustedes más que ustedes otros que les acompañan en la bancada por cierto porque ustedes han sido un partido institucional hasta hace cuatro días que han hecho la coalición jugaban un poco al antisistema

incluso la constitución el estado de derecho la legalidad vigente y por lo tanto puede parece razonable es tan razonable ya que eso tenga un efecto

no estamos de acuerdo con la fecha del veinticinco de octubre como día del país vasco

un nuevo debate un nuevo debate que creemos que no conecta en estos momentos directamente con las necesidades que tiene la sociedad porque hacer un debate público para derogar esta ley creemos que llevaría solamente a evidenciar nuevamente la diferencia y el desacuerdo suscribo íntegramente esta declaración del señor aburto usted ha venido a esta tribuna y ha dicho nada más empezar lo que nosotros queremos es derogar y echar abajo esta ley un ejercicio magnífico de consenso

por qué una votación legítima del anterior parlamento es una imposición y lo que ustedes van a hacer aquí no lo es o sea como está el pnv en la pomada

entonces se impone eso es una visión muy suya muy parcial de la realidad

le quiero decir otra cosa también a mí se me hace muy difícil entender cómo en el mismo momento en el que parece que estamos intentando aproximar en un diálogo

de verdad de los que interesa al país de cómo mantenemos la sanidad la educación las políticas sociales cómo influenciamos el empleo

cómo estudiamos nuestra arquitectura institucional por cierto todo eso se puede hacer gracias al estatuto

y bastante contradictorio quiero tomarle la palabra cuando usted dice esto va a durar un minuto porque

ustedes estaban absolutamente de acuerdo pero qué paso que poco después estos señores meten una moción y entonces hete aquí que les entra a ustedes el vértigo a ver si nos van a robar la bandera del nacionalismo a ver si con esto empiezan a arañar

no pensando precisamente los intereses del país vasco no pensando en el interés del partido nacionalista vasco ese es el gran error que han cometido ustedes y eso es lo más grave de lo que han hecho ustedes que no han puesto el país por delante teniendo el gobierno sino al partido nacionalista vasco

la central nuclear de santa maría de garoña se ha convertido en un símbolo de fuerza en un símbolo de poder de ese poder que es ejercido con soberbia de ese poder que busca innecesariamente el conflicto y la confrontación entre la ciudadanía para el partido popular y muy especialmente para

llevar a españa al pasado es el objetivo y además cuenta con esa inestimable entusiasta y activa colaboración del señor aznar solo así se entiende

como central nuclear operativa siga creando inseguridades y alarmas en relación a su cierre definitivo los señores

quieren dejar bien claro quién ocupa el gobierno de españa y quién y manda y para eso la derecha de los recortes ha decidido que la ciudadanía ponga en su vida un poco más

aunque en la actualidad sea una energía excedentaria y fácilmente sustituible por renovables el señor rajoy considera y no solo en este asunto

allá los ciudadanos que se lo hubieran pensado antes que él es devoto de santa rita de lo que se da no se quita y que si el país quería derecha

nuclear esta es la actitud de rajoy y de soria

que en las últimas horas estén haciendo el ridículo más espantoso con plazos que se les pasa o que incumplen o quizás las dos cosas y con nuclenor a su vez dando más pasos para su cierre y a la vez echando un pulso al gobierno y ofreciendo el desmantelamiento de la actividad

y de una reducción en las exigencias de seguridad lamentablemente al gobierno del partido popular todo le da igual y su obsesión

contra las energías renovables y a favor de la energía nuclear en el interés y la preocupación del gobierno de españa no está ni la necesidad energética ni la seguridad ciudadana ni mucho menos la voluntad mayoritaria de la ciudadanía alavesa y vasca

desde la formación del gobierno rajoy todo lo que acontece entorno a la central nuclear

está plagado de oscuridad contradicciones y despropósitos porque fue el gobierno rajoy el que le cerró el paso a nuclenor cuando anunció que como consecuencia de una nueva tasa para el combustible tendría que pagar ciento cincuenta y tres millónes de euros a lo que nuclenor dijo no

para que nuclenor continué porque a fecha de hoy nadie del gobierno rajoy ha considerado que la ciudadanía debe tener explicaciones de todos estos movimientos y maniobras y para poder ilustrar estas aseveraciones veamos algunas fechas y datos

con revocar la orden ministerial del anterior gobierno socialista

en dos mil trece el seis de septiembre de dos mil doce expiraba el plazo para que nuclenor solicitara la renovación de la explotación y no lo hizo entonces el ministro soria se enfadó abroncó a endesa

y amenazó con ofrecer la central a otros operadores el dieciséis de diciembre del dos mil doce la central se desconectó de la red eléctrica

el seis de julio es la fecha prevista para el cese definitivo de la explotación de garoña sin embargo hoy en vez de estar más cerca de su cierre volvemos a estar ante la amenaza

y todo esto porque el dieciséis de mayo hace unos días el gobierno del partido popular saltándose toda precaución y rigor urgió al consejo de seguridad nuclear a que informara favorablemente a la renovación por más tiempo de la explotación

los miembros del consejo de seguridad nuclear propuestos por el partido popular han dicho que sí a esta petición y los propuestos por el partido socialista

esta decisión forzada por el gobierno de rajoy y de quienes siguen su criterio es de una enorme gravedad y por ello la ciudadanía debe saber algunos importantes detalles el primero de ellos que el gobierno ha imposibilitado al consejo de seguridad nuclear el cumplir con plazos y procedimientos establecidos para su pronunciamiento también que los técnicos del consejo de seguridad nuclear llevaban más de tres mil horas de trabajo invertidas en la elaboración del informe

en una dirección que el gobierno rajoy ha forzado canjear en unos pocos días en sentido contrario y en un gran alarde de irresponsabilidad

la finalidad de la solicitud ya que ni piden producir energía eléctrica ni piden que se pronuncie

algo que es totalmente inédito en la historia de las centrales nucleares que se ha provocado la reunión por cuatro veces en una semana del consejo de seguridad nuclear para analizar numerosos informes técnicos y jurídicos requeridos con urgencia y creando con ello las peores condiciones para sus resultados

que no se está cumpliendo con las prácticas nacionales e internacionales en materia reguladora en una solicitud de renovación de un reactor nuclear de más de cuarenta años de antigüedad que aún no se han incorporado las instrucciones técnicas complementarias emanadas de las pruebas de resistencia el accidente de fukushima que costarían una gran cantidad de dinero que tampoco se ha incorporado el plan de acción nacional remitido

en diciembre de dos mil doce que llevaría aparejado una importante inversión que sigue pendiente la ampliación de estudios e inspecciones a la vasija de garoña

de defectos aparentemente similares a los identificados en la vasija de la central nuclear

costes señoras y señores

la importancia de la independencia el rigor y el respeto

reguladores como garantes de la seguridad nuclear y radiológica justo todo lo que hoy falta en garoña en fukushima se concluyó que

humanos incluso concluyeron algo más y es que los fallos regulatorios y de supervisión fueron de tal gravedad que la catástrofe hubiera podido producirse también en ausencia

natural aquí y gracias al gobierno del partido popular parece que seguimos ese camino

suficiente y necesario para su estudio y evaluación por cierto en japón hay un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares que quieren concluir en dos mil treinta estamos ante un escándalo político

por el empecinamiento ideológico nuclear del partido popular y por un supuesto botín de beneficios para nuclenor si se atendieran a todas sus exigencias estamos ante el escándalo de un gobierno que instrumentaliza al consejo de seguridad nuclear en favor de intereses económicos de dos empresas eléctricas

y radiológica estamos ante un escándalo político que rompe con criterios y buenas prácticas en las solicitudes de renovación de la explotación nuclear

porque nadie sabe dónde puede acabar estamos ante un escándalo político porque el gobierno del partido popular y nuclenor saben que para poner a punto garoña se necesitan más de cuatrocientos millónes de inversión precisamente por quienes no están dispuestos a pagar ciento cincuenta y tres

hasta hoy esgrimido por nuclenor para solicitar el cierre de garoña estamos ante un escándalo político porque el gobierno oculta cómo se va a conseguir esa ahora porque no explica qué ha cambiado o qué va a cambiar porque no explica si para materializar su empeño de seguir explotando garoña va a cambiar las tasas

o todo a la vez la ciudadanía se pregunta qué pasa aquí si es que nadie va a explicar por qué las expectativas de lucro de nuclenor que hace unos meses no existían ahora han reaparecido de la mano de rajoy estamos ante un escándalo político porque españa tiene superávit de energía y no se necesita garoña para nada

porque españa tiene capacidad técnica investigadora y empresarial para producir energía renovable que rajoy y soria intentan que no sea rentable estamos ante una barbaridad un atropello al que este parlamento

ajeno que hay que parar y rectificar y para esa causa quiere contribuir esta moción exigiendo entre otras cosas el cierre definitivo de la central

con lasaportaciones del partido nacionalista vasco y de bildu que conforman una enmienda transaccional y que será la que los socialistas votaremos

orain dela gutxi egunkari batean agertutako titular batekin las eléctricas españolas casi doblan el margen de beneficio de las europeas

consiguieron situar sus márgenes en el seis coma setenta y ocho por ciento en el conjunto del año dos mil doce mientras que las grande eléctricas del viejo continente eon enel

dejaron este ratio en el dos coma sesenta y dos por ciento titular hau

pedro solbes miquel roca ángel acebes fernando béquer

vamos a pasar a explicar cuál es la posición de upyd en este asunto nosotros pensamos que la decisión del gobierno central anterior es decir del gobierno socialista de zapatero de cerrar la central nuclear de garoña un error estratégico estamos de acuerdo por lo tanto con el contenido de la editorial de el país publicado hace una semana

un error estratégico pensamos que fue una decisión demagógica populista sectaria claramente equivocada errónea innecesaria y que fue tomada porque el gobierno de

anteponer determinados intereses partidarios a los intereses de los ciudadanos nosotros pensamos que en españa se ha venido haciendo mucha demagogia

ideológico antinuclear o nuclear obviamente también ha habido y lo hay ideológico antinuclear pensamos que se ha hecho debate ideológico en lugar de debate técnico o al menos debate político pero debate político basado también en argumentos técnicos de esto que habitualmente falta en españa se ha hecho

sin datos con medias verdades o incluso con falsedades se ha llegado a decir que la central nuclear de garoña se cae a pedazos cosa que es

en ocasiones parece que uno nace ya antinuclear y no puede abandonar esa postura bajo ninguna circunstancia es una especie de icono de identidad

excesivamente argumentado o contrastado y esto obviamente es lo más grave en ocasiones es una especie de eslogan forma parte de todo ese listado de cosas que debe ser irremediablemente defendido por cierta izquierda cuando este asunto no es de derechos ni de izquierdas hay destacados

que están defendiendo el mantenimiento de la energía nuclear sin ir más lejos el propio felipe gonzález lo ha venido defendiendo por lo tanto

antinuclear también nosotros siempre hemos dicho que preferimos atenernos a las recomendaciones técnicas y observar la situación política y económica del momento para posicionarnos sobre este asunto y siempre hemos reclamado un debate transparente

adulta que quiere saber recibir información y formarse una opinión sólida sobre las diferentes materias también sobre esta materia siempre hemos defendido un debate objetivo y riguroso sobre energía para que el conjunto de la sociedad pueda conocer los costes y las ventajas reales de cada alternativa y a partir de ahí obviamente tenemos nuestra opinión y nosotros pensamos insisto que la decisión del gobierno de zapatero de cerrar la central nuclear de garoña un error estratégico nosotros pensamos que el retorno de la central nuclear de garoña por supuesto cumpliendo rigurosamente los requisitos técnicos indispensables inversiones exigidas podríaser una buena solución podría ser una solución razonable obviamente cumpliendo rigurosamente los requisitos técnicos

no si no cumpliese las mínimas condiciones de seguridad evidentemente no ni esta ni ninguna otra nosotros pensamos que en el actual mix energético la energía nuclear juega un papel importante si no me equivoco

palabras de una frase dichapor la consejera del gobierno vasco hace apenas dos semanas la señora tapia

mix energético la energía nuclear juega un papel importante y que sigue siendo por tanto necesaria por esto defendemos que la central nuclear de garoña

todos los requisitos exigidos y todas las condiciones de seguridad que sean necesarias podría seguir funcionando es la solución económica más razonable obviamente cumpliendo estricta y rigurosamente

que sean necesarias desde luego es falso que sea una central nuclear que se caiga a pedazos como algunos han llegado a decir esto es falso esto es poco

otra cosa efectivamente y aquí podemos estar de acuerdo con una mayoría de grupos es el vodevil al que hemos asistido durante los últimos meses cuando el gobierno de zapatero decidió cerrar la central un error estratégico

y el partido popular se unieron en una campaña a favor de su continuidad después de las elecciones cuando el partido popular esperaba que nuclenor

para prorrogar la explotación es decir inversiones de reposición y en seguridad la empresa dejo pasar el plazo porque según aseguró la planta no era rentable no dijo que no era segura dijo que no era rentable el pasado septiembre endesa e iberdrola propietarias al cincuenta por ciento de la central

hasta dos mil diecinueve garoña alegó entonces que los impuestos que preparaba el gobierno la llevarían a pérdidas económicas por eso paró en diciembre y descargó

corrige esta posición y pide una prórroga estamos de acuerdo por lo tanto seguramente con una mayoría de grupos

ha tratado de chantajear al gobierno para poder disfrutar de determinados beneficios y para tratar de recibir determinados privilegios

lo que cabe exigir al gobierno central es que no se deje chantajear es decir creo que cabe exigir al gobierno central lo que plantea nuestro

ad hoc para ninguna central nuclear que no aplique la existente de forma espuria que no realice interpretaciones tramposas de la normativa vigente para beneficiar a determinados intereses particulares que no haga nada de esto el gobierno no puede hacer nada de esto y es lo que pedimos en nuestra enmienda

personalizado que no ceda ante ningún tipo de presión o amenaza y que actúe con claridad y transparencia es decir que piense en el interés del conjunto de los ciudadanos y que no se deje chantajear por ninguna empresa una cosa es que toda empresa pretenda alcanzar o quiera tener expectativas de lucro

es comprensible y es razonable las empresas están para eso y otra cosa muy condenable y rechazable que nosotros condenamos y rechazamos es que el gobierno pretenda impulsar normativas ad hoc o plantee estricciones o privilegios para algunos

no estamos de acuerdo es un tema sensible que preocupa a los ciudadanos y estos tejemanejes

en privado al parecer por cierto en pleno debate sobre la ley de transparencia promulgan una ley de transparencia que no es tal y mientras tanto se reúne el ministerio

sino todo lo contrario a que los ciudadanos se sientan seguros de las decisiones que se toman

es que el ministerio de industria ha dejado pasar un plazo clave a favor de la prórroga de garoña

solicitar la prórroga el gobierno debía modificar una orden ministerial y la nuclear pedir esa prórroga antes del uno de junio no se modificó

es el penúltimo enredo porque lo último que hemos sabido es que nuclenor pide al parecer formalmente el cierre de la central nuclear de garoña aunque eso sí nuclenor ha manifestado que si se produjesen cambios normativos que así lo permitiesen

una renovación de la autorización de explotación y es ahí cuando nosotros décimos al gobierno no se deje usted chantajear no cree normativa ad hoc y por eso

sentido nuestra enmienda por eso nuestra enmienda dice lo que dice por eso proponemos que este parlamento inste al gobierno vasco alejado de debates ideológicos

a mantener las exigencias de seguridad y por tanto las inversiones necesarias

pudiera si fuera el caso seguir funcionando pero cumpliendo obviamente esos requisitos y al gobierno le décimos chantajear no engañe a la ciudadanía sea usted transparente y claro no cometa

no cometa tejemanejes ahí está nuestro punto número dos de nuestra enmienda instamos al gobierno de españa a no crear normativa ad hoc para ninguna central nuclear

ni a realizar interpretaciones tramposas de la normativa vigente para beneficiar determinados intereses particulares ni a conceder ningún tipo de beneficio fiscal entre comillas personalizado a que no ceda ante ningún tipo de presión chantaje o amenaza
siempre y en particular con este asunto con claridad y transparencia por lo tanto nosotros votaremos nuestra enmienda gracias eskerrik asko maneiro jauna

el destino es irónico y en estas ironías que hoy seis de junio que debíamos estar empezando ya a contar la cuenta atrás del cierre de garoña nos faltaría simplemente treinta días casi casi como san fermín estemos levantando acta de todo lo contrario de la resurrección

por resucitar garoña con evidentemente la connivencia del gobierno del partido popular y de su ministro de

estuvimos hablando el mismo tema hace aproximadamente dos meses y medio a finales de marzo

uno la extraña ausencia en la votación del alcalde de vitoria sobre la que luego volveré y otra

estamos todo el día hablando de garoña cada tres meses planteamos el tema de garoña y dijo algo parecido como esto está resuelto ya el seis de julio se cierra y no hay nada más de qué hablar como quejándose de que estuviéramos cada tres meses más o menos enmendando

señor barrio el tiempo nos ha dado la razón porque yo le contesté diciendo que había mucha gente en este país

que podía haber cualquier tipo de negociación oscura entre el pp y nuclenor para evitar ese presunto cierre del día seis

podríamos hablar de muchas cosas podríamos recordar la vejez la obsolescencia la antigüedad de garoña podríamos recordar

del reactor nuclear de garoña pero los nacionalistas vascos como hemos visto que en madrid

izaskun bilbao diputada nacionalista preguntaba

su opinión después de los resultados del test de resistencia que promovieron las autoridades europeas tras el accidente de fukushima

que esta central no resiste terremotos de la intensidad que exige el regulador

y que tiene deficiencias en la custodia y protección del combustible gastado en caso de pérdida

y finalmente se habían detectado deficiencias en los planes de emergencia ante una catástrofe nuclear

de una central diseñada para operar durante veinticinco años y con cuarenta y uno años de actividad

hacían que concluyera como todos pensábamos mejor dicho como algunos pensaban la vida útil el seis de julio pero parece que se va a prolongar nosotros hemos estado de acuerdo con parece que al final la lucha anti garoña es de lo poco que une a bildu nacionalistas y socialistas hemos estado de acuerdo con la propuesta del señor prieto

en términos alaveses y esta enmienda dice que el parlamento vasco insta al gobierno de españa a hacer partícipes a los ayuntamientos vascos afectados por la proximidad a la central nuclear de garoña de las ventajas del plan

y de cualquier otro plan de ayuda que se aprobara para beneficiar a los municipios cercanos ante un cierre definitivo de la central nuclear hay que destacar también que

municipios juntas generales ayuntamientos todos hemos estado en contra y evidentemente la decisión del ministerio del pp ha sido en contra de estimamos que en gran parte de la mayoría de la población pero sobre todo de casi casi el cien por ciento de todas las instituciones vascas y alavesas y vuelvo al tema anterior

un plazo más para garoña y aquí parece que encabezan todo lo contrario su diputado general dice que espera que un día venga el ministro soria para explicarnos la prueba de garoña visita que no tenemos fe en que se produzca

alcalde de vitoria también es en su vida pública profusamente anti garoña pero yo quiero recordar que en la votación de hace dos meses y medio se ausentó justo cuando llegó el momento de votar yo señor maroto le animaría a que hoy si se queda en la votación y si

o abstenerse pero la ausencia de su voto en el pleno

poco extraña estamos todos en contra de garoña bildu nacionalistas socialistas y creo que también

quédese hoy y vote en contra de la prórroga del ministerio

gracias señora presidenta consejero señoras y señores parlamentarios

al partido nacionalista vasco permanentemente decir que está en contra de garoña en este último cuarto de hora cuando ha sido el gran puntal de nuclenor

juntamente con la bbk quienes han sido los garantes

trabajando y funcionando durante tanto tiempo el poder económico ese pnv económico y aquí el pnv

de la vida política y desde luego qué le voy a decir al señor ramírez escudero en ese sentido

ninguna posición del gobierno de españa de iberdrola de nuclenor

esas posiciones están perfectamente justificadas explicadas y por mucho que el señor prieto trate de descalificarlas y de otros

sobre la central nuclear de santa maría de garoña y garoña está parada desde el dieciséis de diciembre de dos mil doce se paró se descargó el combustible esa es la realidad todo está igual se trabaja por el cierre

siete debates en la pasada legislatura dos en este mismo período de sesiones el último el pasado catorce de marzo hace dos meses y pico

que regula las proposiciones no de ley dice que la mesa podría declarar no admitida una proposición no de ley reiterativa en el mismo período de sesiones bien esto es una moción

es decir estamos ante el incumplimiento del reglamento del parlamento vasco en este mismo período de sesiones hemos tratado la misma iniciativa

así que yo pido a la mesa que clarifique el criterio porque está bien claro

que hemos tratado en este mismo período de sesiones hace dos meses y pico

artículo ciento diecisiete punto dos del reglamento artículo ciento ochenta y dos punto tres del mismo reglamento

ahí estamos un objetivo que yahemos visto cuál es ya hemos ido analizando cuál es es reiterativo no hay más que ver la iniciativa y la proposición no de ley y desde luego la enmienda transaccional

hace dos meses y pico fue aprobada es decir nueve debates sobre lo mismo

para qué ya sabemos para qué porque las posiciones del pnv y las posiciones del psoe son injustificables

la central nuclear de santa maría de garoña históricamente para qué es este debate

a nivel estatal a nivel de partidos políticos o a nivel de gobierno esa es la única clave de este debate que todos ustedes nos plantean garoña les importa muy poco y desde luego les importa desde hace muy poco sería desde dos mil once

la posibilidad de más de cuarenta años de vida de las centrales nucleares en ese debate parlamentario de la ley de economía sostenible ustedes justificaron la vida de santa maría de garoña por más de cuarenta años ahí mismo y en el resto de centrales nucleares españolas es decir

desde luego no vamos a reproducir los argumentos que ya hemos barajado

dos meses y pico garoña trabaja por su cierre ustedes lo están comprobando

en relación con esa cuestión se haga sobre criterios técnicos sobre criterios de seguridad de gestión de viabilidad que impongan el consejo de seguridad nuclear y las agencias internacionales de energía

es lo que hemos estado hablando hace dos meses y seguimos

parece que no ha cambiado nada aquí nos movemos nosotros en esa cuestión garoña trabaja por su cierre entre las decisiones cualquiera que se tome se haga con el máximo nivel

informe técnico y en función del consejo de seguridad nuclear esa es la cuestión es decir

se ha convertido en un símbolo es verdad usted empezaba así su intervención

de sus propias contradicciones porque está santa maría de garoña abierta cuando en dos mil nueve

la pudo haber cerrado porque zapatero le dio una prórroga a santa maría de garoña o sea esas

ustedes han prorrogado la vida útil de santa maría de garoña ustedes

más allá de cuarenta años y le recuerdo que muchas ya van a cumplir sesenta años de la misma

tienen permiso para sesenta años en el plazo que les ha dado en muchas centrales de la misma

no en relación con garoña sino en relación con tratar de arremeter contra el partido popular nosotros lógicamente

en este debate reiterativo que se nos plantea en la cámara votaremos en contra de la proposición y de la enmienda transaccional

que se ha traído a la cámara que ha firmado el grupo bildu

partido socialista el grupo nacionalistas vascos pediremos votación separada del punto en lo que tiene que ver con que los municipios vascos afectados

de empleo que se aprobó en dos mil nueve eso lo hicimos también en el pasado pleno

en relación con este tema reiterativo reiterado y demagógico que el partido socialista nos trae a la cámara
y pediremos esa votación separada muchas gracias eskerrik asko

señora presidenta señor maneiro ciertamente el debate sobre la central nuclear de santa maría de garoña y el debate sobre la energía nuclear es un debate político porque la energía es una opción es un recurso una necesidad

y es una opción que políticamente socialmente ciudadanamente hay que resolver hay que tomar posición al respecto

gobierno socialista tomó la decisión del cierre de la central en el año dos mil trece y el partido socialista

abandonando progresivamente la energía nuclear por considerarla una energía de alto riesgo de altísimo coste y por considerar que este país estaba avanzando y evolucionando junto con otros países en las energías renovables en otras fuentes energéticas que tengan

de menos daño para las generaciones futuras para el futuro de la humanidad y sobre todo pensando en que los residuos radiactivos como todo el mundo sabe son de una destrucción casi imposible son de una longevidad tremenda

también tremendo y esto hace que haya una conciencia y que esa conciencia se vaya manifestando en la sociedad yo no sé si la energía nuclear es una cuestión de izquierdas o de derechas porque puede haber personas en la derecha

que consideren en este aspecto que la energía nuclear no es una opción de futuro y puede haber personas en la izquierda que consideren otra cosa usted ha citado como cita de autoridad a felipe gonzález yo le diré que felipe gonzález efectivamente es un ciudadano

por toda su historia pero no deja de ser un ciudadano con un voto igual que yo e igual que usted a la hora de tomar una decisión sobre la energía nuclear y él tendrá esa posición individual y particular pero el partido socialista tiene esta

sea más o menos de izquierdas o de derechas la energía nuclear lo que sí sé es que la energía nuclear su abandono es una opción de progreso y esto es indiscutible usted no lo puede discutir y menos titulándose

en fin usted que es progreso rebautizado en el progreso

y la energía nuclear obviamente es mirando al futuro una energía de retroceso una energía que nos hipoteca excesivamente

en relación al señor barrio usted me ha dejado perplejo porque

un alarde de frivolidad y de desprecio a la ciudadanía extraordinario usted es un representante del partido popular y es su partido el que ha provocado este debate y es usted el que sale aquí y el que tiene que explicar esas maniobras absolutamente oscuras por las cuales

y después le abren el paso a nuclenor son ustedes los que tienen que explicar

por los técnicos en el cierre de la central en menos de diez días

la reunión del consejo de seguridad nuclear en cuatro ocasiones y les inunda de informes técnicos y jurídicos para tener que tomar una decisión

la seguridad son ustedes los que tienen que explicar por qué no se han puesto en marcha

ni las decisiones tomadas en la unión europea en relación a la seguridad nuclear por qué esa vasija todavía

porque en realidad se estaba ya planteando el cierre cuando ustedes están planteando la reapertura son ustedes los que tienen que plantear por qué están forzando que nuclenor se mantenga en esta explotación de la central nuclear de santa maría de garoña cuando saben que nuclenor ha dicho que no quiere no le es rentable y que la única forma de que se mantuviera al margen de seguridades sería sobre la base de que el gobierno fuera capaz de recomponerle aquellas expectativas de beneficios que nuclenor tiene puestas

de garoña usted ha hecho hoy un acto de desprecio en este parlamento que

en su réplica porque seguramente son incorregibles pero usted ha hecho un acto de desprecio en este parlamento a la ciudadanía a la ciudadanía alavesa

que está preocupada y muy preocupada por si la maniobra del gobierno de españa lleva al mantenimiento de la explotación de la central nuclear o no

el valor no ha tenido el coraje no ha tenido la capacidad política de explicar eso aquí retrátese que usted tiene que dar aquí

de sus decisiones políticas en vez de enredar con historiales y con cosas reglamentarias y con aspectos ni tan siquiera tangenciales sobre el problema político que estamos hablando tenga el valor y el coraje de

responder por la decisión de su gobierno que es una decisión infame que va a llevar un revolcón en este parlamento porque no se merece otra cosa

que la inmensa mayoría de la ciudadanía alavesa y vasca está totalmente en contra de esta nueva maniobra de su gobierno responda a eso

uno de los argumentos que se utiliza aquí en este discurso a la hora de argumentar las posturas sobre garoña parece ser que antinuclear es un tema ideológico y de pancarta yo solo quiero recordar

alemania su sistema energético eléctrico deje de funcionar con energía nuclear en italia berlusconi convocó un referéndum

dejar de utilizar la energía nuclear esto no es un tema ideológico o de pancarta

tampoco es un debate simplemente

señor maneiro usted cuando dice la frase que lo que reivindican es un debate técnico y riguroso sobre la energía eléctrica

debate técnico riguroso y energía eléctrica en el estado español eso es un oxímoron es imposible

porque luego critica los tejemanejes que existen claro por eso no hay un debate técnico

tejemanejes que existen entre lo público y lo privado en ese sector y tampoco es un debate técnico en el sentido de que si hoy en estos momentos se decide desconectar de la red eléctrica

nada está asegurada la cobertura eléctrica en estos momentos en el sistema

esta misma primavera por llamarle de alguna manera a lo que hemos pasado con las lluvias y los vientos que han existido en el estado español y que se han tenido que desconectar los parques eólicos y hasta centrales de ciclo combinado de gas como es el caso de boroa o como son los tres grupos que existen en castejón

por qué porque la energía nuclear funciona en continuo y se saturaba la red ahora bien no se preocupe

porque si hemos dicho que existe un oligopolio en el sistema de producción y comercialización

en el transporte existe monopolio red eléctrica española una empresa en su día pública hoy en día privatizada al ochenta por ciento ya se puso también a un ex ministro en su dirección al señor atienza

y lo que va a hacer y lo que está pidiendo es que haya más líneas de alta tensión para dar cabida a toda la producción totalmente excedentaria que existe en estos momentos en el sistema eléctrico ya tendremos ese debate aquí también es como proponer que una carretera que está saturada de coches viejos y contaminantes en vez de hacer un plan de movilidad

y pasarlos al transporte público lo que hay que hacer es más carreteras

en estos momentos en españa porque en definitiva

trasladar en nuestra primera intervención las decisiones están tomadas y están tomadas en despachos ni siquiera en los parlamentos ni siquiera la ciudadanía tiene la posibilidad de tomar esas decisiones y yo entiendo que para el partido popular este debate sea muy incómodo

de que se mire el reglamento y nos diga si este debate se podía tener o no se podía tener

no está claro que se vaya a cerrar garoña desde luego yo no lo puedo entender y eso ya es una visión particular

un año más de prórroga se pide que se tome una decisión que se debería

se tome en tres semanas y con las presiones que los propios miembros del consejo de seguridad nuclear han denunciado

y es un marrón para ustedes traer este debate y tenerlo aquí en este parlamento y sobre todo tenerlo

porque estar gobernando contra la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de araba y de gasteiz tiene que ser muy duro

de la prorroga de la vida útil de garoña y a la vez estar votando en contra de la propuesta de cierre de garoña

foral de araba y el ayuntamiento de gasteiz que toman decisiones en contra de la voluntad mayoritaria

y de sus ciudadanas el otro día salió

del gobierno vasco con el título energía y medio ambiente el sesenta y dos por ciento de la ciudadanía vasca

está a favor del cierre inmediato de garoña no quiero ni pensar cuál sería el porcentaje si eso se hace en araba y se hace en gasteiz

sí gracias presidenta en primer lugar confirmar que efectivamente en nuestra opinión ha habido un incumplimiento del reglamento tal y como ha planteado el señor barrio

y que ya se debatió este asunto en forma de proposición no de ley lo cierto es que a penas hace diez días la mesa de este parlamento echó para atrás una moción planteada por upyd en relación a la lucha contra el fraude y el redimensionamiento

institucional y del sector público empresarial con los votos por cierto del partido popular por lo tanto efectivamente en nuestra opinión sí que ha habido un incumplimiento del reglamento en este caso se permite que esta moción trate un asunto ya debatido en este periodo de sesiones en el caso de la moción planteada por upyd

con los votos por cierto señor carmelo barrio del partido popular y esto también tenemos que denunciarlo usted ha planteado el tema con acierto efectivamente tengo que ratificar porque tenemos también que defender los derechos del grupo parlamentario de upyd por lo demás en fin yo ya he planteado todo lo que tenía que plantear en

efectivamente este es un debate político por supuesto que sí como todos yo lo que he dicho en mi primera intervención es que se ha hecho debate ideológico

o al menos debate político pero debate político basado en argumentos técnicos y muchas formaciones políticas durante demasiados años han hecho de este asunto pura demagogia se han olvidado de las recomendaciones técnicas y han ido al eslogan al icono o a la pancarta y esto es lo que nosotros hemos dicho efectivamente el señor hablaba de empecinamiento ideológico nuclear

que también ha habido en este país un empecinamiento ideológico antinuclear por lo tanto política sí pero en un asunto como este especialmente hay que lógicamente atender a qué es lo que dicen los técnicos en la materia y con todo eso pensar seriamente si efectivamente en españa podemos prescindir a día de hoy de la energía nuclear y a día de hoy no se puede prescindir de la energía nuclear este es un hecho y upyd no tiene ningún problema en defender esto

en álava en san sebastián o en madrid a día de hoy y por encima de demagogia la energía nuclear necesaria en españa y esto hay que reconocerlo ya digo la propia consejera señora tapia

la energía nuclear juega a día de hoy un papel importante y no podemos dar la espalda a esta realidad a día de hoy esto es así y en todo caso

de los ciudadanos defender su bienestar y también decir la verdad y decir la verdad y decir como se ha planteado por algunos grupos

algo así como que la central nuclear se cae a pedazos o compararla con fukushima es una falsedad y es una manipulación y los ciudadanos no se merecen estén representados por partidos políticos o por políticos que no dicen la verdad hay que decir la verdad la central según lo que dicen los técnicos en la materia

no se cae a pedazos en absoluto y a día de hoy la energía nuclear es importante en el mix energético y por lo tanto no podemos prescindir de ella esta también es una realidad en todo caso ya digo nuestro posicionamiento está perfectamente explicado

de totalidad que seguramente no se llegará a votar queremos instar al gobierno de españa a mantener las exigencias de seguridad y por tanto las inversiones necesarias

seguir funcionando si fuera el caso que cumpla todos los requisitos de seguridad si no los cumple cerrarse si los cumple en la situación actual lo mejor como decía el editorial del país hace una semana es que siga nosotros estamos de acuerdo y por otro lado efectivamente denunciar el vodevil habitual en la política española y en relación especialmente con este asunto y por eso instamos al gobierno de españa a que no se deje chantajear por eso instamos al gobierno de españa a no crear normativa para ninguna central nuclear ni aplicar la existente de forma espuria ni a realizar interpretaciones tramposas de la normativa vigente para beneficiar determinados intereses

personalizado o a la carta y a que no ceda ante ningún tipo de presión chantaje o amenaza y actuar siempre y en particular con este asunto con claridad y transparencia cosa que habitualmente el gobierno de españa pues efectivamente

yo creo que no es ningún debate político por una sencilla razón porque no estamos debatiendo

una central nuclear que tiene nombre propio ubicación cercana y mucha antigüedad si hablamos del tema nuclear sería un debate político o técnico pero hablamos de un debate de la seguridad

de garoña yo creo que ha quedado clarísimo si usted lee los cinco puntos de la enmienda que hemos firmado

olvídese de la política nuclear estamos hablando de una central cercana peligrosa vieja y antigua no hablamos de la política nuclear de ningún gobierno

no es que no hay centrales hoy estamos pidiendo que cierren una central muy cercana muy peligrosa y ya amortizada

usted ha frivolizado un poquito el tema yo entiendo que en su postura pues puede que solo les quede

y decía que todos estábamos utilizando el asunto de garoña para arremeter contra el pp en absoluto nosotros nos encantaría que garoña estuviera cerrada

pero es que nosotros cuando arremetemos contra el pp es para garantizar

la seguridad de toda la gente que vive cerca de garoña no tenemos ningún interés ni de arremeter con el pp ni contra el alcalde vitoria ni contra

desde el punto de vista de que algún día se pueda cerrar mientras no se cierre evidentemente no tendremos nada garantizado en torno a la garantía no queremos arremeter contra ustedes queremos que se cierre y como ese cierre depende de ustedes en madrid pues no nos queda más remedio que arremeter contra ustedes pero la intención no es esa la intención es simplemente

los que vivimos cerquita de garoña también ha dicho usted antes que garoña trabaja por su cierre señor barrio pues no entiendo como usted puede afirmar que garoña trabaja por su cierre porque eso mismo

pues ha habido cambios sustanciales en el presunto o presumible

y por último decía que es un debate reiterativo también lo dijo el día catorce de marzo y estamos todos de acuerdo es un debate reiterativo pero es que yo creo que reglamento al margen cuando un grupo de ciudadanos

tiene que luchar porque se cierre entonces si el reglamento lo permite imagino que volveríamos a traer otra vez este asunto al parlamento vasco aunque seamos conscientes de que puede que no sirva para mucho y yo por último para los que van a votar

les diría simplemente una cosa muy normal muy humana todos nos acordamos todos tenemos en la resina las imágenes impactantes de fukushima no hay que ser catastrofista ojalá nunca ocurra nada parecido pero imagínense si algún día pudiera ocurrir algo parecido

yo creo que ya es un argumento importante para no votar que no al cierre de garoña besterik ez eskerrik asko

debate estéril y debate improcedente reglamentariamente hablando

separadamente esta iniciativa esta enmienda de transacción no nos deja votar por puntos nos dejó votar hace dos meses y pico

no sé señor prieto consejos vendo y para mi no tengo eso no puede ser

dónde ha estado durante todos estos años dónde ha estado señor prieto

la pegatina antinuclear del partido socialista obrero español esa la tengo que recordar la tengo que recordar puesta en funcionamiento de las centrales nucleares en españa almaraz primero mil novecientos ochenta y tres presidente del gobierno felipe gonzález almaraz segundo mil novecientos ochenta y cuatro presidente del gobierno felipe gonzález ascó primero mil novecientos ochenta y cuatro presidente del gobierno felipe gonzález ascó

ya sabemos quien es el presidente del gobierno cofrentes mil novecientos ochenta y cuatro

ustedes han sido los generadores los implantadores

es que es un monumento a la hipocresía señor prieto un monumento a la hipocresía el que despliegan ustedes y el partido nacionalista vasco en esta cuestión

a parte de la apertura de las centrales nucleares la decisión del gobierno de españa del señor zapatero de no cerrar

sino de prorrogarla hasta el dos mil trece pudiéndolo haber hecho en dos mil nueve es decir ustedes han mantenido

ustedes han fortalecido la posición

ustedes en una enmienda en el senado con ciu con el partido nacionalista vasco

en el marco de la aprobación de la ley de economía sostenible una enmienda que posibilita la ampliación de la vida útil de la central nuclear en españa más allá de cuarenta años es

santa maría garoña señor ramírez escudero pero no está tan vieja y cómo podían

esa enmienda cómo podían aprobar esa enmienda que amplia el plazo a más de cuarenta años de una central nuclear eso se llama señoras y señores parlamentarios

se llama pura hipocresía y pura contradicción y a mí me acusaban de frivolidad en la defensa de las posiciones que debo que defender las de el gobierno de españa y el respeto a las decisiones de los órganos nacionales e internacionales de seguridad y de viabilidad de las centrales nucleares

mezcla suya de hipocresía y de contradicción señora presidenta no voy a perder mucho tiempo más en esta cuestión

claro el señor maeztu ha dichoel debate para nosotros es muy incómodo

nosotros yo este debate lo he hecho pues nueve veces

ha sido testigo de muchas de ellas pero ustedes sí que se mueven

se pronuncia ahora sobre santa maría de garoña y sobre

y todavía su partido no ha sido capaz de condenar el secuestro y el asesinato brutal

de josé maría ryan ingeniero del proyecto de central nuclear

una víctima señor maeztu por trabajar por un proyecto de central nuclear y eta sentenció que

de acabar en españa con la energía nuclear esa era la forma usted eso hoy en su partido no lo condena

lo cierto es que hemos registrado esta moción sin

esperamos que aunque vayamos a perder la votación podamos ganar el debate y sirva al menos para dar testimonio de cuál es nuestra posición en esta materia que a nosotros ciertamente nos parece muy importante básicamente lo que queremos hacer con esta moción es denunciar la política cultural sectaria de este gobierno vasco esto es lo que básicamente quiere hacer esta moción que nosotros hemos planteado hemos discutido sobre la materia en comisión

esta moción después de haber interpelado sobre el asunto a la consejera aquí presente lo que básicamente queremos hacer con esta moción al menos desde upyd

sectaria de este gobierno que ha empezado a aplicar desde sus inicios porque además estamos seriamente preocupados de que esta política sectaria en materia cultural pueda ser también trasladada al resto de

la asociación de escritores de euskadi en la que se congregan algunos de los autores más importantes de euskadi escriban en castellano o en euskera y residan en el país vasco o residan fuera perderá este año la subvención del departamento de cultura que dirige la señora

a la plataforma de escritores en lengua vasca y las razones de esta decisión política tienen que ser explicadas la propia consejera lo explicó en comisión a nosotros no nos convenció sino todo lo contrario y por eso hemos traído esta moción lo cierto es que unas asociaciones suben y otras bajan a unas se las financia más a otras se les financia menos

y a otras todo lo contrario la crisis económica que sufrimos les sirve para ver incrementados sus recursos esta es la política cultural sectaria que está impulsando en estos primeros meses el actual gobierno y que nosotros queremos denunciar algo similar ocurre en el sector de los productores vascos

que percibió el año pasado mientras que la otra plataforma ibaia la otra plataforma del gremio verá aumentar sus fondos públicos

hasta los ochenta mil euros la asociación de productores vascos nació hace

y ha desplegado un buen trabajo durante todos estos años el gobierno decide laminarla por lo tanto lo mismo unas asociaciones ven incrementados sus recursos públicos y a otras se les lamina

de la fundación en honor al poeta bilbaino blas de otero y a la histórica sociedad liberal el sitio de bilbao que el año pasado recibió

sorprende el fuerte incremento a los editores en lengua vasca quienes incrementan lo percibido

lo mismo unas asociaciones son castigadas otras asociaciones son premiadas por la política cultural sectaria de este gobierno a unos se les premia y a otras se les castiga en la lista negra

también está la federación de libreros de euskadi en fin así está el patio nacionalista ejercicio evidente de sectarismo dirigismo

decisiones absolutamente inaceptables que solo eh bildu comparte solo los más talibanes del lugar es decir eh bildu comparte esta política absolutamente sectaria del actual gobierno vasco pretenden marginar a los grupos culturales que trabajan en castellanos y premiar

pretenden marginar a determinadas asociaciones y pretenden premiar a sus amigos todo lo que no sea nacionalista es sospechoso y debe ser laminado la consejera dijo en la comisión tengo que recordarlo otra vez porque así lo dijo y ahí está y quedará en este parlamento como cosa dicha de esta consejera debemos defender nuestra cultura

está grabado y dicho por la consejera luego dijo que se había equivocado y que no quería decirlo lo cierto es que a usted del alma decir debemos defender nuestra cultura

la cultura de sus amigos cuál es nuestra cultura la cultura nacionalista y todo lo que no sea nacionalismo es otra cultura es cultura española el viceconsejero dijo estar preocupado por los ataques a la cultura vasca

otro sectarismo inaceptable en una democracia otra muestra de sectarismo la cultura vasca es la cultura nacionalista

la cultura vasca es únicamente la que se hace en euskera la cultura vasca es únicamente la que hacen sus amigos todo lo que no hagan los nacionalistas es cultura española

cómo va el asunto en absoluto todo lo que se hace aquí es cultura la hagan los nacionalistas o la hagan los que no somos nacionalistas

que también obviamente puede ser todo eso es cultura vasca y tratar de contraponer cultura vasca a cultura española es un ejercicio inaceptable de sectarismo y un profundo ejercicio antidemocrático en fin ahí está nuestra moción

la transaccional que efectivamente hemos firmado con el grupo popular y con el grupo socialista nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna